testuan esaten denean por permitir que se ausentara el consejero ba ez dela zuzena

se está descabezando el departamento esan nahi genuen erdaraz

interpretatu da dejar sin responsable hau

hasta ahora habíamos escuchado eso de váyase señor gonzález lo que jamás habíamos sido testigos

no se vaya que lo denuncie también a la fiscalía puestos a hacer el bobo

politikoa da koldo mediavillari erantzuten idatzitakoan esaten genuen bezala nuestra crítica y denuncia no se refiere a que aburto el consejero de empleo y políticas sociales se vaya

totalmente descabezada a mitad de legislatura una irresponsabilidad del gobierno en su conjunto del lehendakari y de los miembros del departamento

hauek daude la principal preocupación de la ciudadanía vasca es el paro sesenta y cinco por ciento la siguiente la situación económica cuarenta por ciento y la tercera la pérdida de la calidad de las condiciones laborales treinta y tres por ciento el setenta y uno por ciento de los trabajadores y trabajadoras de araba bizkaia y gipuzkoa cree que sus condiciones laborales han empeorado un suspenso a los servicios sociales pensiones lanbide y políticas de vivienda hau da errealitatea hauek dira aipatzen ditugun tamainako erronkak

andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok arratsalde on en laenmienda del partido popular instamos al lehendakari a tomar las medidas pertinentes para subsanar las deficiencias detectadas en la gestión del departamento de empleo y política sociales

al objeto de que se cumplan los objetivos que tiene encomendados la realidad de los datos pone de manifiesto el fracaso en el cumplimiento de los objetivos y fines que tiene encomendados el departamento

este relevante departamento del gobierno vasco realidad que desde el partido popular hemos puesto de manifiesto y sobre todo en los últimos

utzi du desde el partido popular consideramos que el lehendakari ante esta situación como máximo responsable del gobierno vasco tiene

no se están cumpliendo los objetivos marcados para esta legislatura los resultados en relación a la empleabilidad son escasos

inferiores a los que presentan otras comunidades autónomas

en los que se ha perdido empleo se ha perdido a un ritmo superior al de otros lugares en el último mes en

un seis coma dos por ciento y en el país vasco un tres coma cuatro por ciento

de afiliación a la seguridad social tenemos menos afiliados que al principio de la legislatura al principio de la legislatura en el mes de diciembre del dos mil doce teníamos

y el último dato es que tenemos ochocientos ochenta y cuatro mil afiliados se ha dicho aquí una de las principales preocupaciones de los ciudadanos vascos es el paro y la situación económica

arantza quiroga en una interpelación dirigida al lehendakari donde ocupamos en el año dos mil trece el último lugar y que

el último dato nos sitúa en uno de los indicadores más bajos de la última década dónde están las políticas reales que tienen que ver con el impulso de la actividad emprendedora o que luego partidas en relación a estas políticas no se ejecutan

se encuentra que la ejecución presupuestaria no tiene nada que ver con los créditos consignados inicialmente por lo tanto no era el empleo

de las prioridades de este gobierno vamos a los resultados de la intermediación laboral cifras oficiales dadas por

cuatro por ciento cuando gestionaba las políticas activas y eso que la transferencia de las políticas activas era una oportunidad por no hablar de la política de vivienda que no da una verdadera respuesta a las necesidades de los ciudadanos

absolutamente insuficientes consideramos que antes esta realidad el lehendakari

es muy deficiente y manifiestamente mejorable

ahí están los datos sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis

cantidad de cobros indebidos o de pagos indebidos ochenta y seis coma siete millónes de euros de los cuales todavía no se han recuperado sesenta y nueve millónes de euros datos oficiales veinte coma nueve millónes de euros en irregularidades y fraude y abusos datos oficiales

remitidas o que se van a remitir una falta absoluta de claridad que generan frustración y confusión en aquellos que reciben estas

la inacción del gobierno para corregir el rumbo del departamento de empleo

ez duela ezer egin saileko norabidea zuzentzeko no apreciamos voluntad real de este gobierno y del señor aburto en adoptar medidas efectivas

detectadas dos años de gobierno y está sin aprobar la reorganización de lanbide y su rpt dos años señor lehendakari dos años señor aburto cuando la rpt

es un instrumento fundamental y esencial para que lanbide cumpla sus objetivos la actitud de este gobierno en este departamento

gobernu honen jarrerak agerian uzten du aurrera ihes egin nahi duela ha fracasado la convocatoria de la mesa de diálogo social hasta que ustedes finalmente la han convocado porque han claudicado al chantaje de quienes no querían sentarse en la misma dos años perdidos

para tapar la ineficiente o ya diríamos inexistente gestión a tenor de los resultados

inmediatas sean las que sean para corregir el rumbo y la falta de resultados en un departamento clave del gobierno vasco

el señor aburto se produzca cuanto antes voy a pasar a comentar las iniciativas original la iniciativa planteada

y que al permitir la salida del consejero ante los retos tan graves que se presentan y la denuncia del comportamiento irresponsable visto lo que he explicado consideramos que esta iniciativa se queda corta y por eso hemos presentado

instando a que el lehendakari toma las medidas necesarias inmediatas para corregir el rumbo y subsanar la deficiente gestión que se está produciendo en este departamento en ese sentido también consideramos

el gobierno vasco tiene que hacer frente a rentos y desafíos importantes pero

oposición creo que tenemos que dar un paso más y viendo los resultados de este departamento la falta de voluntad de este gobierno de corregir el rumbo y la inacción en muchas cuestiones relacionadas con el departamento de empleo y asuntos sociales un departamento relevante y con la gestión de lanbide consideramos que urgen

en ese sentido usted lehendakari como máximo responsable del gobierno vasco le instamos

estamos asistiendo a un espectáculo lamentable de acción política y de ejercicio de lo que tiene que ser la oposición

a un gobierno de qué va este tema qué es lo que hoy estamos debatiendo estamos debatiendo la iniciativa planteada por eh bildu o estamos ante un pleno monográfico sobre las políticas impulsadas por el departamento de política sociales y del gobierno vasco de qué va esto si alguien me lo puede porque lo que han planteado tanto la representante de eh bildu como la representante del partido popular no está en el orden del día de la sesión de hoy esto qué es una especie de

el departamento responsable de las políticas sociales el empleo y la vivienda

no entiendo absolutamente nada y nosotros no vamos a sumarnos a este juego de hacer oposición de cualquier manera me parece ya digo

lamentable si hay que analizar las políticas de este departamento no tenemos ningún problema y podríamos decir mucho pero no creo que corresponda al debate de hoy ni que responda a lo que la iniciativa planteada por eh bildu

en general analizamos todos los días la política impulsada por este gobierno y de cada uno de sus departamentos y hacemos oposición todos los días del año pero ya digo que la iniciativa planteada por eh bildu es muy concreta y aquí lo que se pretende es que este parlamento denuncie la irresponsabilidad del gobierno precedido

por permitir la salida del consejero el señor aburto y por otro lado denunciar el comportamiento irresponsable del consejero de los viceconsejeros y de varios altos cargos

en otras tareas que es lo que está planteado en esa iniciativa nosotros no le vemos

no vamos a apoyarla vamos a apoyar nuestra enmienda que vale para este consejero

y que vale también para el conjunto del gobierno vasco que es el responsable de impulsar todas las políticas de acción pública en beneficio del conjunto de la ciudadanía por lo tanto hemos presentado esta enmienda que dice lo siguiente

y de varios miembros de su actual equipo el parlamento vasco

el departamento de empleo y políticas sociales entre otros el perfeccionamiento del funcionamiento de lanbide la creación de empleo estable digno y de calidad la inserción laboral de las personas beneficiarias de la rgi el fortalecimiento del sistema vasco de protección social la lucha contra la pobreza la exclusión social y la precariedad y la aplicación de una política de vivienda que atienda a las necesidades reales de los ciudadanos todos estos retos y desafíos exigen un trabajo permanente y constante y nunca se terminan de alcanzar del todo corresponde al departamento corresponde al gobierno y corresponde consejero mientras esté en su cargo y en cuanto se vaya corresponderá al consejero que venga y al equipo con el que venga ese consejero en fin por lo tanto creo que haya mucho que decir me imagino que los que vayan a irse en el momento en que se vayan serán sustituidos por otras personas que tratarán de realizar

de extraordinaria importancia por lo tanto a los presentes al señor aburto a los miembros de su equipo lo que hacemos nosotros es recordarles cuáles son

que traten de alcanzarlos mientras estén en su cargo y en cuanto se vayan vendrán otros y por lo tanto esos otros también le recordamos cuáles son los retos que

a ese departamento creo que no cabe mucho más que decir porque

a un inicio de debate que es realmente

la iniciativa que trae hoy bildu habla de la irresponsabilidad del gobierno ya se ha explicado aquí por la marcha del consejero de empleo y algunos

quiero recordar que en la comisión del seis de febrero de dos mil trece en la que el consejero desgranó las líneas maestras de actuación de su departamento

que se sentían enormemente responsabilizados por lo mucho que la sociedad espera demanda y necesita de este departamento por lo tanto a la vista de lo que presenta hoy

si el objeto de esta intervención encaja con la pretensión o con el propósito de los proponentes tampoco sé si eso responderá

la visión que el grupo socialista tiene sobre el asunto que aquí se ha traído como objeto de debate en el día de hoy vaya por delante que el hecho de que un consejero

un partido se organice como considere oportuno no nos merece a nosotros mención especial ya hubo un consejero de sanidad que accedió al mismo cargo al que aspira el señor aburto y no recuerdo que en aquel entonces hubiera habido polémica alguna por el hecho de que el partido nacionalista

sus recursos humanos de otra manera por lo tanto máximo respeto a la decisión que cada partido toma en el orden interno en cuanto a su organización

no obstante para analizar realmente

constituye un problema de primer orden como se plantea o no primero habría que ver y revisar qué ha sido hasta ahora la gestión del consejero de empleo en aquella comisión fundacional por así decirlo porque era la que abría paso a la legislatura en el departamento se hablaba del plan de reactivación del empleo

de un fondo de solidaridad por el empleo que sonaba muy bien el fondo de solidaridad duró cinco minutos luego hablaban también de que pese al entorno de dificultad las empresas de economía social el movimiento cooperativo estaban demostrando gran capacidad de adecuación a la situación

de que cayera fagor y de que las subordinadas de eroski y de fagor

en los medios hablaba también de fomentar el sector cooperativo y a día de hoy vemos cómo la ley de cooperativas se va retrasando y se va retrasando y demás

la patronal planteó una guía de relaciones laborales propia de la edad media se hablaba de impulsar

escudándose en que en fin hay unos recursos de la autoridad vasca de la competencia de la abogacía o sea que lo de las cláusulas sociales que se decía en aquel entonces

promover espacios de encuentro y de agentes para crear planes territoriales y locales de empleo ya se ha dicho antes con relación a los emprendedores planes de emprendimiento planes locales de empleo

para nada de la rpt bueno en fin ni mencionar en definitiva

que ha sido básicamente en los consejos de gobierno gestionar y asignar los recursos presupuestarios para los diferentes programas es decir el trabajo

más genuino de un administrador que básicamente no tiene más que llevar acabo eso pero es que a nosotros nos parece que ese no es el trabajo de un gobierno que debe de liderar acciones de gobierno y qué diremos qué diremos en materia de vivienda quiero simplemente decirle que en materia de vivienda

y por ejemplo decir que en el plan director de vivienda para el alquiler se planteaba en el dos mil trece quinientos cincuenta viviendas y hicieron setenta y nueve

en fin se podrían seguir dando datos sobre la falta de alcance y de cumplimiento de objetivos que el propio

se había planteado en su momento pero no creo que el señor consejero pueda él mismo en su fuero interno celebrar

de lo que aquí se pueda decir uno mismo sabe realmente hasta dónde ha llegado y no creo que el señor aburto pueda estar satisfecho de la faena que ha cuajado pero el planteamiento que hacía bildu

y en este sentido hay que decir que el gobierno cómo ha concebido

pues a mi modo de ver el gobierno lo que hizo fue básicamente

iniciaba otra andadura para lustros hay que ir acomodando diferentes elementos y por lo tanto lo que ha sido la acción de gobierno la acción de liderar ha quedado supeditada digamos a acomodarse en los resortes en los ámbitos de poder esto es lo que nosotros hemos visto porque claro es que en materias de políticas de empleo no somos de hoy es decir esto tiene toda una génesis

cómo fue la transferencia de políticas activas de empleo cómo se estuvo jugando frívolamente y con despecho con ella

señor consejero en el último pleno de control venía a sugerir que la rpt no está hecha porque quizás la tendríamos que haber hecho los socialistas cuando gobernamos

para cambiar la naturaleza jurídica de lanbide de ente público derecho privado a organismo autónomo si efectivamente ese era

y ahora resulta que el problema viene desde entonces

plantea partido nacionalista vasco algunas cuestiones saben ustedes que la ley de vivienda es una proposición de ley que trae el grupo socialista y que por ejemplo un tema bastante emblemático es aquel de la expropiación temporal en situación de desahucio a los bancos bueno pues el partido nacionalista enmendó

que eso no era de recibo y lo elimina y sin embargo en el congreso de los diputados presenta una enmienda a una moción de izquierda plural en el que coincide

contemplar la expropiación temporal de uso de inmuebles propiedad de la banca las viviendas afectadas por procedimiento de desahucios

en el congreso de los diputados y haber conseguido la anuencia y el apoyo del partido nacionalista pero es que lo que están planteando en el congreso de los diputados aquí lo niegan

por lo tanto entendemos que en materia de empleo no se cumple nada de los objetivos trazados por el propio consejero en materia de vivienda no se han alcanzado ni de lejos los objetivos pese a que la demanda en alquiler ha ido en aumento y

por todas estas razones y a la vista de que el gobierno cuando ha sido interpelado ha sido expuesto a la crítica de la oposición sus argumentos han sido no

es que no podemos cumplir acuerdos parlamentarios porque estamos pensando en cambiar no sé qué marco jurídico es decir siempre

por todas estas razones entendemos que al final todas estas políticas que se han seguido solo pueden responder

o a una característica de ambas o bien por desinterés o bien por incapacidad como nosotros tenemos una triple duda sobre si es

o tres las cosas que hay es por lo que nos vamos a abstener

dónde designa a sus personas en los puestos de representación institucional y otra cosa es que efectivamente a día de hoy pues no podemos compartir con los proponentes el hecho de que la marcha del señor aburto vaya a suponer un gran quebranto para una gestión que realmente

portavoces aquí han dicho pues francamente no creemos que vaya a suponer un gran quebranto
incluso hasta podría ser hasta deseable nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna

gauzak era batean edo bestela egiteko porque esto de amagar y no dar

aunque haya abstenciones de por medio en definitiva se ha entrado a evaluar la gestión a poner nota y en definitiva de una forma camuflada decir estamos censurando a este gobierno pero

aunque pueda haber un punto político de crítica legítima cuando se exagera es que se pierde la perspectiva

les hubiera recomendado y además tuve personalmente

la vía la de la proposición no de ley en la que se califica de irresponsable

y la distinción entre lo que son electos y los que son cargos de nombramiento lo que es un equipo no hay un equipo no va a haber un equipo descabezado un gobierno descabezado

titular de un departamento que marche a otra institución o se marche a casa el gobierno tiene la responsabilidad de sustituirlo

entonces vamos a llamar a las cosas por su nombre yo creo que siendo legítima la pregunta incluso la crítica

negativa o positiva que puede hacer cada cual yo creo que se ha confundido el registro y la vía porque se ha ido a descalificar o a calificar de irresponsable al gobierno y al lehendakari y también de irresponsables a los afectados y me parece

no es correcto horregatik eta goizeko

cuando herrigintzaz ari garenean o cuando se está hablando de política y de participación porque no hay que personalizar porque

para hablar de juan mari aburto ya tendremos

cuando proceda y cuando toque con sus proyectos y demás pero él tiene una trayectoria vital muy ligada al servicio público

es evidente que cuando toma la responsabilidad del departamento lo hace al cien por ciento y es del equipo del lehendakari

proceda el cambio se procederá con naturalidad aquí se ha citado el caso de iñaki azkuna iñaki azkuna siguió ejerciendo de consejero hasta que llegó el pleno de nombramiento de alcalde en el que tenía la mayoría

dónde está el problema si se quiere desfigurar y se quiere

se monta otro pleno monográfico y hablamos de las políticas de empleo hablamos de lanbide de la política de vivienda

hori zen izenburua el correon aburto dejará el gobierno no mucho más allá que navidades unai sordok

porque teniendo en cuenta la situación de interinidad en la que se encuentra el departamento de empleo y políticas sociales tal y tal beraz kontutan izaten ari dira ere ez dela

y denuncia no se refiere a que aburto el consejero de empleo y políticas sociales se vaya no es nada personal berriro esango dut sino a la irresponsabilidad de dejar una más importantes totalmente descabezada en mitad de la legislatura cuando la situación social es preocupante hori da guk egiten dugun

desde luego ya han sido analizadas por el grupo popular no sé si por el señor maneiro pero por el grupo popular sí han sido analizadas y ahí están los resultados y ahí están los datos no sé si usted ha tenido

son evidentes y los resultados de la gestión ahí están en el incumplimiento de los objetivos marcados al principio de la legislatura

falta de resultados en la gestión como hacía referencia y un caso absolutamente gráfico es la gestión en lanbide creo que esto ha sido compartido por

es que usted haya querido reducir esa crítica que en otras ocasiones ha hecho en este departamento a la gestión del señor

o reivindicando cuestiones concretas pero es que voy más allá incluso creo que algunos de los compromisos adquiridos se han incumplido

las cantidades necesarias para que los ayuntamientos percibieran las cantidades necesarias para llevar a cabo esos planes de empleo y para que salieran las convocatorias correspondientes ahí están las ayudas de emergencia social una de las consignaciones

las necesidades que tienen los ayuntamientos ahí están las ayudas previstas para la conciliación también insuficientes y que no han dado cobertura a las solicitudes

y consignado para el ejercicio dos mil quince

que queden sin atender a eso me refería con los incumplimientos o los compromisos que no se han cumplido por lo tanto

la mala gestión la deficiente gestión están ahí los datos lo avalan y cómo no

cuando además tiene la evidencia de los datos una gestión que

que acabo de señalar cómo no vamos a hablar de esa gestión mire al grupo popular y al partido popular ni nos parece bien ni nos parece mal que el señor aburto sea candidato a la alcaldía de bilbao es que es una cuestión en la que ni entramos ni nos parece bien ni nos parece mal ha sido una decisión del partido nacionalista vasco

sus decisiones en las asambleas correspondientes los órganos pertinentes en base a los criterios que ustedes hayan considerado nosotros lo respetamos pero consideramos que visto lo visto

se va a ir y se va a ir con un parte importante de su equipo pues igual entre esas medidas que le instamos al gobierno vasco y al lehendakari

de todos y como persona que dirige el gobierno y que hay que tomar medidas necesarias y de forma inmediata

en la gestión de un relevante departamento del gobierno vasco y en la gestión de lanbide pues igual una de ellas tiene que ser ya que el señor aburto se vaya cuanto antes

de este departamento y la gestión en lanbide es que se produzca la salida del señor aburto cuanto antes por eso le hemos instado al señor lehendakari a que se tome las medidas pertinentes
para que se corrija ese rumbo que desde luego creemos que no es el acertado eskerrik asko garrido andrea

le quiero hacer notar que efectivamente conforme decía el señor egibar nosotros no queríamos participar de un sucedáneo de moción de censura porque creíamos que no era

a nadie le debiera de llamar la atención el hecho de que en esta cámara se pase revista y se haga un repaso a lo que es la acción de gobierno porque es básicamente la actividad y el trabajo que aquí desempeñamos todos los que estamos en la oposición por lo menos

el hecho de que en función de la iniciativa que ahora viene aquí se esté repasando la acción de gobierno

o de asombro porque es de lo que estamos hablando decíamos en la intervención primera que un partido puede efectivamente establecer como asigna los recursos

soberanamente y nadie es quién para decir lo contrario pero claro al calor de este debate lo que se trata es de saber si realmente este abandono del puesto

a nuestro juicio no hay tal quebranto porque sonará fuerte o no pero señor aburto

ha estado en funciones a la espera probablemente de ese momento y por lo tanto todo el transitar de la legislatura hasta el día de hoy

por supuesto que no yo no voy a negar como el valor al soldado sus intenciones sus propósitos y sus esfuerzos pero los hechos los resultados son los que son son los que son y es más parece que le molesta que la oposición en el papel que le corresponde haga hincapié justamente en aquellos déficits que en esta materia son abultados le molesta pero es que realmente tampoco usted

por mostrar una actitud digamos que pueda reconciliarnos con su figura porque a día de hoy a día de hoy señor consejero si usted realmente ya es el candidato del partido nacionalista vasco para la alcaldía de bilbao

aprovechando esa plataforma para hacer su campaña electoral usted debiera de haber ya decididamente haber entrado en la campaña

y haber dejado que efectivamente el relevo se produzca porque todo lo que aquí se está diciendo se comparta todo o parte de los discursos de los diferentes portavoces tiene

y por lo tanto eso seria lo decente a día de hoy

por lo tanto hágase el relevo y haga la campaña que tenga que hacer pero en las condiciones que se corresponden con ese planteamiento pero a día de hoy la situación de interinidad es notable y no puede evitarse porque si fuera

estamos en el mismo punto del que se arrancó en un estado digamos casi vegetativo que no tendrá que ver con su esfuerzo que yo no dudo que habrá sido múltiple

pero no nos hemos puesto de acuerdo aquí los grupos de oposición para hacer este diagnóstico que efectivamente

bastante escaso y bastante pobre en cuanto a resultados por eso digo

se repasa en este asunto y en todos los que aquí se tratan y desde luego de este debate no puede salir bien parado porque estoy convencido señor consejero se lo he dicho en la primera intervención

difícilmente puede estarlo y lo entiendo porque esta es una tarea ingente una tarea titánica y realmente dos años no es tiempo

pero es que en este espacio de tiempo las cosas se han ido como he dicho en un primer momento echando la culpa a otros pensando en que en fin

y en materia de empleo de vivienda pero señaladamente de empleo que es uno de los rubros más importantes hemos perdido el partido

al juicio del grupo popular ante un asunto grave desde luego

político como por las cantidades de las que estamos hablando como se ha dicho ya por parte del portavoz del grupo proponente

de las denuncias sobre presuntas irregularidades

del proceso de contratación de los comedores sociales en la escuela pública vasca durante

se está investigando el reparto por parte de siete empresas de todos los contratos de la educación pública en relación con los comedores escolares y con el catering la autoridad vasca de la competencia ha abierto un expediente para investigar las presuntas irregularidades

autoridad vasca de la competencia ha constatado que desde el año dos mil tres hasta dos mil catorce las empresas adjudicatarias del servicio fueron siempre las mismas

siempre cada uno de esos lotes han conseguido ganarlos las mismas empresas los contratos suman señorías setecientos millónes de euros

aunque la investigación se ha centrado en la última década competencia admite que esta dinámica ya se empezó a producir desde el año dos mil las mismas siete empresas que se llevan los contratos de educación en materia de comedores escolares

se llevan todas las adjudicaciones desde el año dos mil los mismos y siempre de la misma manera

agencia vasca de la competencia la seguridad de ganar que tenían las empresas era tal

por un mayor trozo de la tarta se presentaban únicamente a la oferta de un lote y cada una de ellas se han ido repartiendo siempre los siete lotes de adjudicación

según la propia agencia vasca de la competencia las ofertas no se separaban en ningún caso ni en el uno por ciento del precio tope

aquí siempre se iba al precio máximo las empresas seguramente se han puesto de acuerdo para conseguir los lotes al mayor precio posible como realmente que el que paga es la administración y el dinero parece que cae del cielo pues se ha venido funcionando así desde hace ya casi quince años además

se trata de un comportamiento

y además que esto no haya llamado la atención a los responsables políticos del departamento todavía es más curioso cuando se trata de uno de los contratos más voluminosos

por el servicio catering en los colegios públicos sería según fuentes del mercado en los propios medios de comunicación ha aparecido superior hasta un treinta por ciento superior de lo que

del servicio de comedor en algunos casos supera hasta el cincuenta por ciento los costes que se sufragan

en los comedores de los centros públicos estos hechos podrían haber obligado por tanto al gobierno vasco a afrontar un sobreprecio en estos años de más de doscientos millónes de euros o sea estamos hablando de que aquí se han pagado de más doscientos millónes de euros

más de doscientos millónes de euros si nos remontamos al año dos mil

podríamos hablar ya de trescientos millónes de euros tirados a la basura alguien se los ha llevado en todo caso hay

que tenían la responsabilidad de velar por la mejor gestión de los recursos públicos supone señorías

destinará en dos mil quince a las ayudas de emergencia social

asociación vasca de lacompetencia comunique comunicara en agosto que abriría un expediente sancionador de las siete firmas investigadas las siete empresas privadas investigadas la más afectada sería la perteneciente a la cooperativa mondragón

en dos mil trece se llevó a través de sus tres empresas la mitad de los ochenta y cuatro millónes

que licita educación la mecánica para acceder

de catering tiene una fase previa se ha dicho ya por parte del proponente se ha explicado educación realiza una licitación previa para homologar a las empresas

evalúa los criterios para

la empresa denunciante llevaría más de una década una empresa como ya se ha mencionado el

lleva más de un década intentado acceder sin éxito al contrato de catering pese a que osakidetza el ministerio de economía y hacienda avalan con nota

pero bueno es imposible meter el morro en esa contratación los mismos siete las mismas siete empresas se reparten

cada año de manera sistemática los cientos y cientos de millónes de euros que nuestra comunidad dedica

siempre son las mismas siete empresas las únicas que pasan

y fuentes del sector desde luego muestran su extrañeza por un concurso público en el que las empresas apenas reducen nunca sus precios mientras que en el sector privado la rebaja media para llevarse cualquier contrato en un centro escolar

y el veinte por ciento como mínimo como ya se ha explicado

los hechos expuestos constituyen indicios racionales

en la ley de competencia en caso de confirmarse estaríamos hablando de multas millónarias que podrían llegar al diez por ciento del volumen de negocio de esas empresas según dieron cuenta los medios de comunicación lo hemos denunciado también y se ha tratado por parte de los diferentes medios la empresa denunciante y esto resultó muy curioso y muy llamativo la empresa denunciante adivinó mes y medio antes del fallo de la contrata adivinó ante notario el resultado de las adjudicaciones que firmaba el gobierno vasco acertó tanto las empresas que se iban a llevar

como los lotes que se les iban a adjudicar a cada una de las empresas y eso que el sistema había cambiado había pasado de ocho a diez lotes pero esta empresa la que siempre

ante notario decir qué empresas van a ser las adjudicatarias qué lote se va a llevar cada una y por qué importe acertó de pleno

se hicieron eco de ello los medios de comunicación

confirmada desde luego no puede responder a otra cosa que a la de

entre las empresas adjudicatarias de dicho servicio de comedor resulta obvio desde luego absolutamente sospechoso desde luego que esto pueda ocurrir y que venga ocurriendo año tras año desde hace más de diez años ya se hace quince años sin que

sucesivos responsables del departamento les haya llamado la atención semejante

hay demasiados indicios a nuestro juicio demasiadas casualidades que se vienen produciendo y además hay unos responsables concretos en relación con quiénes son los que

qué laboratorios son los que lo deciden qué personas qué funcionarios

por encima de esos funcionarios estamos hablando de uno de los servicios de contratos más sustanciosos de la administración con importes multimillónarios algo

huele fatal en el proceso de contratación de los comedores podemos estar ante un caso grave podemos estar ante un caso grave de corrupción

y estamos hablando aquí de las contratas de setecientos millónes de euros donde se está pagando un sobreprecio de trescientos millónes de euros siempre a las mismas empresas curiosamente

de lo que pasa a fuera en otras comunidades de que si hay corruptos en no sé donde en madrid el otro las

y lo que está ocurriendo aquí quién investiga quién investiga lo que ocurre aquí podemos estar ante un caso grave en todo caso grave de corrupción de financiación ilegal en todo caso se deben delimitar cuanto antes

dilucidar cuanto antes si efectivamente esto y termino ya responde a estrategias de determinadas empresas que con artimañas ilegales

aumentar y engordar el beneficio propio o si efectivamente aquí ha habido connivencia de responsables públicos responsables públicos responsables políticos eso es lo que tenemos y necesitamos que se nos explique cuanto antes aprovechando que está aquí la señora consejera
esto es muy importante que lo expliquen los responsables del departamento nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

la contratación pública es una de las actividades típicas de la administración y tiene diferentes vertientes jurídicas económicas

tiene que ver con muchos aspectos de la economía también pero tiene que ver sobre todo

la corrupción y todo lo que representa parece que se canaliza fundamentalmente a través de la contratación pública y por tanto

diáfanos transparentes y objeto de todo tipo de controles para evitar que esta

sea reducida a la mínima expresión lo que ocurre es que la iniciativa que nos trae hoy bildu la justifica precisamente insinuando la existencia de irregularidades

de lo que he podido escuchar por parte del señor oyarzabal casi podría decirse que se dan por sentadas que existen y yo creo que la actividad parlamentaria

un ápice de prudencia un ápice de prudencia a la hora de establecer juicios porque efectivamente

de sospecha y de dudas sobre un procedimiento que tiene ya muchos años que no ha dado lugar problemas episodios alimentarios que efectivamente supone un contingente importante más de noventa mil niños comen todos los días

y se habla de las irregularidades precisamente a partir de la existencia de una empresa que parece que queda excluida de las licitaciones desconozco los motivos porque no he llegado a ver esos expedientes con tanta profusión y detalle

se llevan el gato al agua que son las que

con los lotes que salen a concurso hay especialidades en la actividad económica

presentan un universo empresarial muy definido además de la empresa digamos recurrente que por cierto

según tengo entendido con resultado desestimado es decir que

y parece ser que hasta el momento los tribunales no han establecido la existencia de las mismas por lo tanto que nuestro debate flote

sobre el ambiente de unas irregularidades que están por demostrarse pero que a la hora del debate parece que son se dan por ciertas pues nosotros creemos

que es un enfoque con el que no podemos estar de acuerdo

pero es que por otra parte además de esa empresa el universo empresarial cómo está constituido

en fin en una modesta experiencia que tengo como licitador a contratos de la administración en especialidades muy concretas el ámbito y el universo de empresas que coincidían en esas plicas

eran los mismos siempre efectivamente era mecánica de suelos no había más empresas que las que había y

probablemente las barreras de entrada para las empresas que quieran concurrir a ese mercado pues sean importantes desde el punto de vista de la inversión probablemente yo no lo sé

porque debo de confesar que no es una materia propia de las áreas que habitualmente llevo pero en fin algo sé de contratación pública

es todo mejorable y hay áreas de mejora sin haber esclarecido la existencia o no de irregularidades cómo podemos plantear

y claro que en nuestra enmienda señor lazarobaster es

muy neutra no dice nada y la de transacción es muy generalista porque creemos

está funcionando bien entendemos que no ha habido más quejas que las que en todo caso un empresario legítimamente

por cierto el expediente de la autoridad vasca de la competencia lo inicia el propio interesado es decir

un expediente de oficio él lo ha pedido y se lleva a cabo y precisamente todas las cautelas que incorpora ese expediente precisamente son en su favor para favorecer el buen éxito de ese expediente

recurrente esto es lo que tenemos que decir en relación a estas cuestiones relativas a las irregularidades

hablar de ellas sin mayor concreción lo que hacen es enturbiar el debate y hacer creer que efectivamente todo está en fin en los días que vivimos

es fácil creer la existencia de irregularidades aunque estén por demostrar porque como vivimos en un entorno

pues es fácil aceptar la existencia de irregularidades en la contratación porque parece moneda de uso corriente pero es que están por demostrar y por lo tanto plantear cambios de procedimiento

sobre la base de irregularidades no demostradas nos parece poco prudente nos parece que es en todo caso hacerlo al calor de una iniciativa legítima de este empresario que quiere

que efectivamente se esclarezca cuál es el procedimiento pero claro si resulta

hay prácticas restrictivas de la competencia y esas empresas por lo que sea han formado un cártel pues entonces tendrán

de esas prácticas restrictivas de la competencia y lógicamente las sanciones que pudieran devenir pero entonces estamos hablando de prácticas restrictivas de la competencia hechas lógicamente a espaldas y con desconocimiento de la administración contratante porque si lo que usted plantea señor oyarzabal o lo que plantean los proponentes es que

porque hay una concertación de las empresas de las que el órgano contratante tiene conocimiento pero eso entonces tiene que estar en tribunales directamente

nosotros por supuesto presumimos la buena fe presumimos que todo este procedimiento

a cosas extrañas mientras no se establezca otra verdad material en el ámbito de la jurisdicción o que en el caso de la autoridad vasca de la competencia establezca que hay una práctica restrictiva de la competencia porque si así fuera nosotros estaremos perfectamente

y se sancione como corresponde a las empresas y obviamente pierdan su habilitación para seguir contratando con la administración faltaría más pero solo llegado ese momento

porque mientras estamos hablando de todo esto haciendo creer o sugiriendo entre brumas que existen las irregularidades

porque sería una postura demasiado blanda y pusilánime con un hecho tan deleznable como la corrupción pero es que eso primero tiene que quedar demostrado

está reclamando con toda la legitimidad del mundo tendrá sus motivos y sus razones pero eso tendrá que esclarecerse en los órganos en los ámbitos institucionales que correspondan y una vez sentado los hechos probados entonces

que llevan a cabo estas prácticas restrictivas y si efectivamente hay que inhabilitarles para el futuro y respecto de la empresa

recurrente con todo el derecho del mundo a buscar lógicamente

entiendo que las exclusiones han sido motivadas como no puede ser menos en el derecho administrativo sí cuando se le deniega un derecho a alguien principio general del derecho administrativo es obligado fundamentarlo y motivarlo y doy por supuesto que ha sido motivado

presidenta hablamos de las presuntas y digo

en los procedimientos de contratación de los comedores escolares en la escuela pública vasca empezando por el principio como no podía ser de otra manera

se conoce hace poco más de un mes cuando la autoridad vasca de la competencia anuncia que abre expediente a las empresas adjudicatarias del servicio de catering para los comedores escolares adjudicación que realiza el departamento de educación por haberse repartido supuestamente el mercado de forma fraudulenta se trata

empresas tres de ellas pertenecientes a la corporación

la denuncia parte de una empresa del sector aibak que sistemáticamente queda fuera del reparto y que llega a acertar quiénes van a ser los adjudicatarios de qué lotes

algo que recoge en un documento suscrito ante notario antes de que se celebre el concurso de dos mil once según el comunicado de la autoridad vasca de la competencia existe constancia de que al menos desde el año dos mil tres
hasta el año dos mil catorce isiltasuna mesedez cada una de las empresas investigadas vienen realizando la prestación del servicio
uno de los lotes abiertos por la administración vasca para lograr la concesión esto lo dice la autoridad vasca de la competencia aunque la investigación es por una década

admite que estas prácticas podrían estar produciéndose desde el año dos mil y dice que hay serios indicios de prácticas anticompetitivas y de acuerdos en los precios solo las tres empresas pertenecientes al grupo mondragón se habrían llevado concesiones por más de cuatrocientos millónes de euros en la última década

de presentación de ofertas acordado previamente para repartirse el mercado lo que les habría llevado a obtener precios más altos y por lo tanto habría provocado un perjuicio

pagando por encima del precio real de mercado y también para los usuarios los propios niños cuyos padres habrían estado pagando más por el comedor

el uno por ciento cuando lo normal es que en concursos de este tipo de prestación de servicios las rebajas que ofertan las empresas sean superiores

la empresa denunciante ha asegurado que los precios que ofertaban las adjudicatarias eran un treinta por ciento superior al que se está pagando en los colegios de la red concertada y en los privados por el mismo servicio lo que representaría

de la década investigada cuando llevamos este tema al pleno de control nosotros también presentamos una

le planteábamos a la consejera algunas preguntas que hoy siguen vivas el departamento de educación ha controlado de forma correcta los desarrollos de estos concursos durante esta década

sospechaba que se estaban produciendo prácticas concertadas de precios y de reparto del mercado nunca le resultó sospechoso que fueran siempre las mismas empresas

y además los mismos lotes en fin a esta consejera o a los consejeros y consejeras anteriores evidentemente de los últimos años no le extrañó o a nadie

y prácticamente sin rebajas lo cierto es que estas preguntas evidentemente no fueron respondidas y hoy añadiríamos una pregunta más por qué no se permite la homologación de nuevas empresas en fin esto es extraordinariamente sospechoso

sospechoso al parecer la homologación de nuevas empresas depende de un funcionario de lakua y de un laboratorio externo

de dos personas que durante años y años no han permitido nuevas homologaciones y el departamento de educación al parecer no se ha enterado de nada

ante un caso de corrupción podríamos estar ante un caso de corrupción todo esto es muy sospechoso lo más curioso del tema es que el propio departamento de educación sí permite a esas empresas no homologadas para los colegios participar en otros concursos por ejemplo en las comidas para los campos de trabajo de verano al parecer este sistema de homologación no se hace en ningún sitio y ni siquiera aquí en el país vasco para otros catering por ejemplo a lo que se refiere a las comidas

de educación tampoco lo hacen las diputaciones para las residencias de ancianos o el ministerio de defensa para los cuarteles se les exige tener los requisitos sanitarios en orden y las correspondientes iso pero no pasar por esos procesos inventados educación el caso es que para el curso dos mil quince dos mil dieciséis tienen que convocar un nuevo concurso por lo que es importante que ahora se les marque unas pautas

de uno de los concursos de servicios más importantes si no el más importante de la administración ya que está dotado con ochenta y cinco millónes de euros cada año en fin todos estos datos nos llevan a pensar que todo esto es sospechoso a partir de ahí nosotros planteamos nuestra propia enmienda de totalidad a través de la cual queremos instar al departamento de educación del gobierno a que realice nuevo proceso de homologación de la solvencia y capacidad de las empresas que prestan servicios de catering con una empresa

independiente y especializada este proceso deberá realizarse

de la red pública que la duración máxima de la adjudicación sea de dos años que en el próximo

dos mil dieciséis se fraccionen más los actuales siete lotes de tal forma que se facilite la competencia de las empresas del sector y finalmente que en el próximo concurso la oferta económica no suponga más del sesenta por ciento de la puntuación total de tal forma que se permita primar otros criterios como las condiciones sociales

de productos locales que planteen las empresas del sector en fin esto es lo que nosotros pensamos que debería hacerse el grupo

socialista han firmado una enmienda de transacción que como ya se ha dicho es bastante genérica

no concreta nada ciertamente cuando proponen revisar y reformular el procedimiento por el que se otorga el contrato del servicio de comedor escolar

digamos que están reconociendo que efectivamente en los últimos años

y hay margen de mejora y por otro lado lo que se propone a través de esta transaccional es algo

razonable y defendible por todos que se garantice que la contratación se ajuste

a las licitaciones publicidad y transparencia en los procedimientos

entre los candidatos eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos salvaguarda

y la elección de la oferta más ventajosa una transaccional que puede entenderse que

pero que en nuestra opinión no es lo suficientemente concreta

votaríamos en el caso de que se llegue a votar que no creo pues nuestra enmienda de totalidad que me parece que es más concreta que la transaccional que ustedes han firmado

porque ya finaliza en el año dos mil quince el periodo de vigencia

indudablemente seguro se podrá mejorar siempre se va aprendiendo

a lo que ha planteado el señor maneiro dos años nos parece una duración demasiado corta por dos motivos las empresas adjudicatarias tienen que hacer una gran inversión

por lo que es importante que estas organizaciones puedan tener una seguridad por otro lado la parte más importante de este contrato es la mano de obra

no es conveniente cada dos años generar incertidumbre el gobierno respondiendo al segundo punto de la proposición del señor lazarobaster

en principios de publicidad concurrencia y objetividad y así lo han ratificado con relación a este procedimiento como ha dicho antes el señor itxaso el órgano de recursos contractuales y

en vía contencioso administrativa respondiendo a la tercera propuesta con respecto al número de lotes

hay que tener en cuenta aspectos tales como la orografía la densidad de población distancia entre centros claro no es lo mismo atender un centro escolar en gasteiz

eso creo que es fácil de entender y hay que seguir criterios que fomenten lo máximo la concurrencia y la competencia

a dichos análisis de donde saldrá el número de lotes que tenga que salir con respecto al cuarto punto la regulación de capacidad y solvencia exigible a las empresas esta está regulada de manera estricta por la normativa vigente en materia de contratación con respecto a la quinta propuesta y en algunas de estas también he contestado por ejemplo en el plazo de tiempo al señor maneiro

el servicio en la actualidad aplican el convenio colectivo de empresas de colectividades en comedores escolares de gestión directa dependientes del departamento de educación

y como no puede ser de otra manera las empresas adjudicatarias del próximo contrato deberán aplicarlo también por otro lado el personal será subrogado al igual que se ha hecho en anteriores renovaciones contractuales

ofrece ningún problema con respecto al

como no puede ser de otro modo hay que definir los criterios para concretar cuál es la oferta económicamente más ventajosa si bien respetando en todo caso los principios de publicidad

aquí se han presentado por los grupos criterios totalmente opuestos en cuanto al peso que debe tener

la oferta económica unos quieren que aumente el peso y otros quieren que disminuya con respecto a los puntos séptimo y octavo de la propuesta

y han de estar directamente vinculados al objeto han de ser objetivos han de estar ponderados

y la relación calidad precio de cada oferta hay que hacer notar que en euskadi enabril de dos mil ocho se aprobó

sobre incorporación de criterios sociales ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la administración de la comunidad autónoma

a principios de este año y de la propia legislación estatal en cualquier caso

en la contratación pública es posible si se tienen en cuenta los siguientes principios básicos

para proveer un servicio de no discriminación relación con el objetivo del contrato trato equitativo

cualquier decisión en este sentido debe ser acorde a dichos principios bueno

y a lo que se han referido todas las enmiendas que se han presentado luego los discursos han ido por otra dirección vamos a los discursos

que no tiene absolutamente nada que ver con el discurso el señor oyarzabal lo sabe perfectamente pues bueno esto es lo que precisamente se está dirimiendo por la autoridad vasca de la competencia

y ya veremos lo que hay nosotros no prejuzgamos nada por adelantado y estamos a la espera de lo que salga con respecto

a la intervención del señor lazarobaster

en nuestro primer intercambio usted y yo hemos empezado mal espero quiero creer que estaba usted mal informado

absolutamente intolerables con respecto al tema de la presencia del señor

en esta comisión mire en primer lugar sabe quién

la presidenta de la comisión porque esto estaba previsto hace ya tiempo y dijo que no puede venir que lo posponía o sea que primera cuestión la persona que no permitió que viniese es la presidenta de la comisión que es de su grupo

segunda cuestión y también muy importante después de eso

acordó como se ha visto por el escasísimo período de tiempo que ha habido entre el acuerdo de la comisión y la presentación del señor arratibel que reformulase su petición

para hablar justo de nada de lo que usted ha dicho aquí sino simplemente del tema de la auditoría porque no puede hablar y en eso justificaba su acuerdo la presidenta de la comisión que es de su grupo decía que la autoridad vasca de la competencia dejó claramente

ni en comisión secreta se puede referir a lo que dice el expediente por lo tanto el acuerdo es que venga no a hablar de nada de esto a hablar

algo que está ya perfectamente definido y delimitado en la sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del tribunal superior de justicia del país vasco

pero va a poder hablar de eso y no de otra cosa pero es que además lo más sorprendente es que ya habiendo reformulado la propuesta de comparecencia

secreta pero para qué si nosotros desde el primer momento dijimos queremos que sea pública

si no puede venir a hablar de todo que venga cuando pueda no que venga ahora a contarnos no sé qué cosa que no va a hablar de nada de lo que realmente importa por lo que se ve

todos los discursos de este parlamento que es las presuntas irregularidades

las empresas sobre eso no puede hablar porque resulta que es lo que está en el expediente por lo tanto

o sea se va a hacer para el lunes que viene corriendo prácticamente la respuesta del señor arratibel entra antes de que salga el propio acuerdo pero bueno no sé cuál es no entiendo por qué han mezclado ustedes el tema hoy la moción con lo que es la comparecencia

pretenden esconder porque es absolutamente claro que el pnv no ha gestionado este gobierno no ha gestionado

otros grupos el suyo el suyo es el que más tiempo ha gestionado uno de los grupos que está en su grupo uno de los partidos que están en su grupo por lo tanto no sé qué es lo que pretenden usted

y una serie de sospechas realmente increíbles

tendré que pensar que no es de fiar bueno en cualquier caso el discurso que usted ha hecho

es a las que he respondido yo no tienen coherencia alguna las propuestas

porque efectivamente como está a espera de decisión de la autoridad vasca de la competencia hay ya otras decisiones en otros campos

no se podría hacer otra cosa pero insisto el discurso usted puede hacer el que le da la gana faltaría más pero esas sospechas que ha sembrado oiga que los que han gestionado

ni este gobierno este gobierno lo único que ha hecho es aplicar dos contratos derivados del acuerdo marco

igual que en este sentido el señor oyarzabal le ha pedido a la consejera ha dicho ya que está aquí la consejera

o si no tendrá que esperar a que resuelta la autoridad vasca de la competencia

un órgano creado por una ley de este parlamento

que este parlamento ha creado para que juzgue estas cuestiones

muchas gracias señora presidenta señorías estamos ante un caso

acabará teniendo que dar explicaciones el lehendakari sobre todo esto y seguramente seguramente igual hasta tendremos que hablar de comisiones de investigación

señor itxaso vamos a ver dice que denunciar irregularidades es fácil y sobre todo presumir de que cualquier denuncia a su presumir las irregularidades sin pruebas me lo dice o me lo cuenta

yo creo que datos que son sustantivos sustanciales pero que además datos que ha aportado ya la agencia vasca de la competencia no se trata

de que siete empresas se lleven el gato al agua siempre desde hace quince años y haya una empresa que se ha molestado

se trata de investigar de investigar por qué son siempre las mismas siete empresas las que se llevan siempre los mismos lotes

y al mayor precio posible y segundo se trata de cambiar el procedimiento pero hay que investigar lo que ha pasado oiga que estamos hablando de trescientos millónes de euros de sobreprecio trescientos millónes de euros deja a la operación púnica como una broma al bárcenas y a toda su parentela comootra broma vamos creo que quitando los eres de andalucía del psoe y el caso pujol

como aquí haya un caso como aquí se demuestren irregularidades aquí sí que estamos hablando de la parte del león porque estamos hablando de contratos donde el sobreprecio son trescientos millónes de euros

que el cubierto de los niños en las escuelas públicas está costando a nueve euros el menú diario

que por quince años estamos hablando de más

que igual estamos ante un caso de acuerdo entre empresas para beneficio propio igual

siete empresas que se han puesto de acuerdo para llevarse aquí la pasta

quién ha estado vigilando este procedimiento es que queremos saber quiénes han sido los funcionarios casualmente los mismos desde hace muchísimos años

que es que el partido socialista es el responsable los últimos cuatro años el partido popular no estaba allí

bildu ha dirigido el departamento durante un montón de años

todo esto durante los últimos treinta nos quieren decir ahora los del pnv que aquí vamos por compartimentos estancos y aquí la responsabilidad es de ea

queremos saber quiénes han sido los responsables políticos que han mirado para otro lado queremos saber quiénes han sido los funcionarios que han determinado

quienes han decidido la parte técnica la subjetiva la que decide quién entra y no quién pasa el filtro qué laboratorios

y como aquí estamos hablando de mucho dinero cómo no nos va a preocupar esto

cuántas veces hemos tenido que discutir aquí sobre los comedores escolares cuántas veces hemos discutido aquí sobre la manera de becar a las familias que no pueden asumir el alto coste de los comedores escolares cuántas veces hemos dicho aquí si las cuotas

había que reducirlas si se puede asumir ese coste o no y resulta

que estamos diciendo de dónde se saca el dinero de dónde se recorta para poder pagar el servicio de comedores y que a las familias no les repercuta tantos euros al mes

un treinta un cuarenta por ciento más de los costes reales y a usted señor itxaso le preocupa

es que aquí lo importante es que las empresas como van a hacer una inversión

quince años llevándose esa burrada de millónes de euros

no les han sobrado con creces las inversiones realizadas

las mismas siete empresas se han llevado siempre todos los contratos y aquí ha habido responsables públicos que ha mirado para otro lado porque aquí el denunciante

hoy ayer el mes pasado el denunciante y ha salido en la prensa dice que ya hace dos legislaturas para no responsabilizar solo al partido socialista también a los anteriores

algo olía raro que llevan quince años llevándose los mismos la pasta pero es que además

si me dijesen señores del pnv señores del partido socialista quien firman hoy una transacción

porque ustedes están tratando de justificar lo injustificable aquí

se ha gestionado falta los recursos públicos

es de que se han llevado los concursos los más caros

pero al mejor precio es que se lo han llevado siempre los mismos y al peor precio

señor lehendakari porque aquí la gestión y la responsabilidad sobre la gestión de los recursos públicos
recae en quien dirige los departamentos oyarzabal jauna amaitzen joan

yo es que con la seguridad con la que habla el señor oyarzabal yo creo que su grupo usted mismo

para poner una denuncia por maquinación para alterar el precio de las cosas como usted sabe es un delito con esa certeza y con esa seguridad

lo que décimos es que este o cualquier otro debate que se alumbra sobre la base de que hay una irregularidades que están por demostrar pero que puede que existan si nosotros

en afirmar que si existe una concertación una práctica restrictiva de la competencia que se inhabilite esas empresas para contratar con nuestra administración general

incluso si les tienen que juzgar por la comisión de un delito como el que acabo de citar o les tienen que imponer las multas que corresponda porque ha habido la comisión de esas prácticas no tenemos ningún inconveniente no estamos justificando absolutamente nada lo que estamos diciendo es que al calor de esa sugerencia de esa insinuación

cambios o unas modificaciones que aceptarlas significaría dar por supuesto la existencia de irregularidades que aun todavía

poco prudente nos parece poco prudente porque efectivamente a lo mejor alrededor de un mercado importante como es el de los comedores escolares

tendrán sus intereses harán lo posible por acceder a los contratos y resulta que hay uno que no accede a los contratos pero hasta donde yo sé resulta que en una de esos procedimientos de contratación

exigibles pero que eso sí las montaría en el caso de que resultará adjudicatario hombre

uno tiene que tener ya de entrada todos aquellos requerimientos que son exigibles

parcelar a veces los volúmenes de contratación para dar juego

empresas de otro tamaño de menor tamaño pequeñas o medias ahora bien si los requerimientos

requieren fuertes inversiones lo que no es de recibo señor lazarobaster es que el niño

sirve una empresa pequeña tal y como ustedes plantean tengan otras capacidades menores que los que acceden a lotes superiores pero cómo es eso el interés general no es el interés general para todos todos los niños no tienen que

sus comidas en las mismas condiciones con las mismas capacidades de las empresas licitadoras o unos tienen que tener menos capacidad porque licitan a volúmenes más pequeños eso sí que nos parece

no son de recibo todos debieran estar en las mismas condiciones no en una lotería por la cual si te toca tal empresa como esta tiene menos capacidad pues a lo mejor y por qué las empresas de menor tamaño

no realizan estrategias de alianzas empresariales tan necesarias para también ir conformando el tejido empresarial un poco más fuerte que sabemos que es una de las debilidades

parece que son las mismas se ve que no debe haber más empresas y una es

esperemos a ver que es lo que dicen esos procedimientos porque estamos hablando de la autoridad vasca de la competencia y aquí se ha dicho eso es una creación de esta cámara tiene unos procedimientos tienen una duración

y si efectivamente existe la existencia de esas irregularidades y de haberlas depúrense las responsabilidades a que haya lugar por supuesto lo que décimos

es aventurado y es apriorístico plantear un debate sobre la existencia de unas irregularidades que están por demostrarse sea este el debate o sea cualquier otro que la prudencia es una virtud necesaria en el ejercicio de la política y no se trata de justificar nada ni de amparar nada porque si efectivamente esos procedimientos están viciados de alguna manera aclárense

por prácticas clandestinas contraídas por las empresas que concurren a la legislación pública
pues una vez demostrado caiga el peso de la ley sobre ellos eskerrik asko

su discurso ha sido una auténtica demasía si usted tiene datos para decir lo que dice creo que hace muy mal en no llevar a los tribunales a los que considera responsables creo que está en su obligación hacerlo

con su enmienda que está recogida en nuestra transacción como usted bien sabe por lo tanto usted

como si estuviese haciendo la comparecencia del señor arratibel que no le permite hacer bildu y además se ha convertido usted

y por qué lo hace pero le insisto creo que es una demasía

al gobierno culpable no culpable tendrá que responder mire usted el gobierno ha seguido los procedimientos objetivos y transparentes que está obligado cuestión diferente

que es lo que efectivamente tendrá que dirimir la autoridad vasca de la competencia y en eso estamos todos de acuerdo y que lo dirima y que lo dirima con toda claridad

en ese sentido tengo que decirle que esto no es que lo diga yo que el gobierno lo ha hecho así

mire tribunal superior de justicia sala de lo contencioso administrativo de bilbao sección número de recurso quinientos ochenta y dos barra dos mil doce sentencia número trescientos trece barra dos mil catorce si quiere luego alguno se lo puedo dar

pero es que está aquí no lo digo yo por lo tanto diferenciamos entre lo que ha sido la actuación de la administración y lo que

irregulares de alguna empresa pero eso se tendrá que dilucidar de momento

el señor arratibel va a venir pero no puede hablar de eso no sé si además en secreto tampoco

de otras cosas que ya están juzgadas pero bueno lazarobaster jauna

ez dakit zergatik diozu hori dice no plantean ustedes absolutamente nada oiga yo le he respondido punto por punto a todo lo que usted ha planteado por punto por lo tanto usted sí que no ha planteado nada diferente

por lo visto creo que voy a tener que ampliarlo un poquito con respecto al sexto y al séptimo que es lo que

le he dicho que es posible si se tienen en cuenta los principios básicos siguientes transparencia todos los licitadores deben ser informados de la misma forma y a la vez y todos los requerimientos ambientales deben ser especificados claramente para poder comparar objetivamente las ofertas

los criterios ambientales no pueden ser introducidos de modo que se favorezca a ciertos proveedores por ejemplo favoreciendo productos locales o que se restrinja la documentación a presentar

más relación con el objeto de contrato todos los requerimientos ambientales y sociales deben estar relacionados con el objeto del contrato es decir que no se puede por ejemplo solicitar

la administración debe reconocer explícitamente y aceptar productos que cumplan con los criterios ambientales mostrando certificaciones o documentos equivalentes

todo eso es lo que le he dicho que hay que analizar para poder aplicar lo que usted dice

a todo lo que ha planteado dice que nosotros no décimos nada pues mucho más que usted pero si nosotros

a la que ha presentado el partido popular dice claramente revisar y reformular ya ha dicho porque toca porque termina ahora el acuerdo marco

en los centros públicos de la comunidad autónoma favoreciendo el principio de concurrencia a licitadores

y en el marco de la legislación vigente en materia de contratación pública

en los comedores escolares públicos de gestión directa garantice

publicidad y transparencia en los procedimientos no discriminación igualdad de trato entre los candidatos eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos salvaguarda de la libre competencia en la elección de la oferta más ventajosa mucho más de lo que usted ha dicho muchísimo más

al gobierno que siga igual no al gobierno le estamos reconociendo que según lo que dicen los propios tribunales ha hecho las cosas como están

normativa vigente y también lo que hemos dicho y estamos diciendo y así lo dijo la señora consejera en su intervención

dijo claramente que están analizando todos los pormenores

a la posibilidad del peso de la oferta económica etcétera etcétera

por lo tanto qué aportan ustedes que no hayamos aportado nosotros aparte de sembrar

una serie de sospechas que son absolutamente inaceptables eskerrik asko arieta araunabeña jauna eztabaida